más allá de las legítimas diferencias que mantenemos en otros aspectos a la mayoría de los miembros de esta cámara nos une

y la deslegitimación del terrorismo compartimos unos valores democráticos y el rechazo al terrorismo

esa complicidad política mayoritaria la que buscamos aquí ante quienes persisten con mayor o menor protagonismo en su pretensión de engrandecer la trayectoria de eta

es precisamente la expresión de esa complicidad la que promovemos hoy aquí en este parlamento aparcando

y los intereses partidistas los partidos políticos somos instrumentos al servicio de esa voluntad mayoritaria en la sociedad vasca que apuesta por vivir y en libertad desde esa responsabilidad nos corresponde

poner en valor los valores de la democracia

cualquier manifestación de intolerancia de fanatismo de odio nos corresponde le corresponde deslegitimar

mantener la iniciativa para deslegitimar a quienes buscan a un tiempo glorificar la historia terrorista

y al mismo tiempo participar en la construcción democrática de euskadi

tantas veces como sea necesario para ir deshaciendo todas y cada una de las falsedades construidas por el entorno social y político de la banda terrorista para ir deshaciendo el enorme nudo forjado

es un ejercicio diario constante una responsabilidad compartida que exige de quienes la defendemos

protagonista no es una pretensión teórica sin aplicación práctica es

en la que vive hoy la sociedad vasca ilusionada con un futuro democrático cada vez más cercano perfectamente consciente de que para consolidarse necesita descansar sobre un pronunciamiento claro de rechazo a eta y de reconocimiento a las víctimas

destacados presos de la banda terrorista han cumplido condenas de entre veinte y treinta años

aquellos que un día se fueron a empuñar las armas como buenos patriotas vascos

que ha crecido y evolucionado en un régimen de libertades ese

y se encuentran con una sociedad que ha evolucionado que ha evolucionado a pesar de ellos que procura ser mejor

y la pregunta es y todo para qué

y en ese para nada descansa la necesidad de recuperar la dignidad de la sociedad que no va a ser fácil

que es imprescindible cómo

momentos como este para dejarles bien claro que la democracia les ha ganado

unida a unos episodios que hemos vivido en las últimas semanas de aquellos que se empeñan en llevarnos a un pasado al que no queremos volver

unas imágenes que ya habíamos borrado de nuestras cabezas nos reafirma todo eso en la necesidad de seguir prestigiando los valores y principios democráticos no estamos ante un momento cualquiera

la referencia que ejerce la trayectoria de muchos de esos presos que salen a la calle entre quienes siguen justificando la utilidad de la banda terrorista

muchos de ellos son jóvenes que han crecido enalteciendo

sin renegar de su pasado terrorista en la actitud de esos presos protagonistas destacados de la historia de eta

hay una defensa escondida de su trayectoria terrorista quienes han pasado más de media vida en prisión por asesinar

envueltos en un mutismo y siendo eso grave

sería grave y eso es lo que estamos pidiendo hoy aquí

no sea nuestro silencio no sea

de las instituciones porque ese silencio

la realidad actual en la que vive hoy euskadi y despreciando la ilusión por vivir en democracia que tenemos

ante esto lehendakari las instituciones que representan los verdaderos intereses y objetivos de esta sociedad tienen la obligación de responder democráticamente a los mensajes que se esconden

cumpliendo nuestro compromiso democrático con independencia de otras iniciativas

contribuir también a consolidad un suelo ético en euskadi

que en un momento como el actual instituciones vascas reafirmen el rumbo democrático decidido por la sociedad vasca aquí hoy en esta cámara

por la democracia que hemos hecho la inmensa mayoría de los vascos y deslegitimando discursos y actitudes que pretenden aprovechar

de presos de eta para justificar la existencia y la trayectoria

las instituciones tenemos la responsabilidad la obligación de poner en valor la auténtica realidad de euskadi y su apuesta democrática

defender el camino recorrido a costa de mucho sacrificio los vascos no hemos llegado hasta aquí

revelándonos frente al miedo para nada

los presos de eta que están saliendo en libertad y quienes les reciben

activa protagonista y convencida en la defensa de los valores democráticos y en la deslegitimación del terrorismo

el rechazo a eta y el resarcimiento a las víctimas para poder construir una democracia auténtica en euskadi

resquicio alguno a la justificación del asesinato la intolerancia y el odio que en definitiva tiene

y que necesita ejercerlo manifestarlo y demandarlo ante quienes hoy sigan sin respetarlo

debe encontrarse con el grito democrático de la sociedad vasca que no admite dudas en su rechazo al terrorismo

y que lo exige y lo demanda convencida que solo desde esa exigencia es posible construir un futuro democrático en euskadi

por ello lehendakari le pido que apoye esta moción

que no es del partido socialista que no es del grupo nacionalistas vascos que es de todos los que queremos construir el futuro

en tolerancia y respeto y de dignidad de la sociedad vasca y le propongo lehendakari que sea usted el que lidere este proyecto compartido por la inmensa mayoría de los vascos le propongo aprobar

conjuntamente para que este parlamento refuerce su compromiso con la realidad social en euskadi con el prestigio de los valores democráticos con la necesidad de avanzar en el rechazo a eta

del daño causado eta nunca debió existir lehendakari matar

la sociedad debe recuperarse lehendakari y su recuperación que será larga pasa por este momento

enfrentándonos a nuestro pasado con todas las consecuencias porque solo así podremos mirarnos al espejo

aquella que nunca debimos perder la que emborronaron los mismos que ahora regresan a nuestra tierra y lehendakari no se trata de dobles castigos no se trata de arrinconar a la izquierda abertzale

de una moción que lleve odio le propongo lehendakari que digamos claramente hoy sin miedo que la democracia es el único camino

y que demos un ejemplo a nuestra sociedad que necesita

de un pasado que nunca debió existir y de la determinación absoluta de que nunca consentiremos

nada parecido en el futuro solo es eso lehendakari solo es eso pero tanto

finalmente hemos terminado firmando esta transaccional que se nos ha ofrecido por parte del grupo popular y del grupo socialista una

sinceramente no recoge todo lo que debería recoger y que no es todo lo contundente que debería ser y que creo que no insta de manera digamos suficiente a esta gobierno y al gobierno de españa a hacer

para derrotar definitivamente a eta y las ideas totalitarias que han acompañado a la historia criminal de eta creo sinceramente que no es todo lo contundente que debería ser pero también es cierto que nosotros en esta ocasión no hemos querido dejar

transaccional porque efectivamente muchas delas cosas que recoge este texto son simples principios democráticos que deberían ser firmados y apoyados por cualquiera que se considere

que no es lo suficientemente contundente y no es la transaccional que upyd hubiera redactado y porque creo que no

suficientemente especialmente a los gobiernos al gobierno de españa y al gobierno vasco a defender la justicia a defender la legalidad vigente a cumplir la ley y hacer cumplir la ley creo que está bien o estaría bien que este texto fuera aprobado por este parlamento pero creo que son los gobiernos los que ser lo suficientemente exigentes con eta y con el mundo que ha acompañado a eta para lograr la derrota definitiva e incondicional y nosotros pensamos

no están haciendo ni mucho menos todo lo que debería ser necesario para deslegitimar las ideas totalitarias por lo tanto nosotros vamos a mantener una proposición no de ley registrada hace apenas semanas que todavía no ha sido debatida para instar al gobierno vasco e instar al gobierno de españa a cumplir la ley y hacer cumplir la ley que creo que es lo que debería hacer cualquier gobierno en todo caso nosotros con esta enmienda

que hemos terminado firmando queremos mostrar nuestro compromiso con la defensa de la democracia el estado de derecho con los principios y valores en que se asienta

el respeto al pluralismo político y social y a los derechos de ciudadanía con esta transaccional que hemos terminado firmando queremos mostrar nuestro compromiso con los principios de memoria verdad y justicia no se trata únicamente de que la existencia de eta y las actitudes de la izquierda

sean incompatibles con la convivencia sino que es precisamente

la existencia de eta y lo que ha venido haciendo históricamente la izquierda abertzale y lo que sigue haciendo a día de hoy lo que precisamente rompe la convivencia e impide que tengamos aquí una convivencia democrática plenamente

se apela en esta transaccional a todas las instituciones vascas a seguir y deslegitimando a todos aquellos que pretenden seguir justificando la trayectoria criminal y totalitaria de eta eso es lo que dice el punto cuatro de la transaccional que nosotros hemos firmado

que el gobierno vasco no está combatiendo suficientemente ni está deslegitimando a todos aquellos que pretenden seguir justificando la trayectoria criminal

pensamos que el gobierno vasco no está haciendo en absoluto esa labor

observar qué es lo que ha ocurrido en nuestras calles en las últimas semanas y podemos observar también qué es lo que el lehendakari contestó a un servidor hace apenas quince días cuando le preguntó qué es lo que iba hacer el gobierno vasco para impedir homenajes a

excarcelados si observamos lo que ha ocurrido en las últimas semanas llegamos a la conclusión al menos nosotros que el gobierno vasco no está haciendo todo lo que debería para lograr la derrota definitiva de eta y para deslegitimar sus ideas totalitarias

los que tienen que cumplir esa función defender a la sociedad democrática y defender a las víctimas y el gobierno vasco no está haciendo en absoluto esto esta es por lo tanto nuestra opinión y evidentemente nosotros décimos con el partido popular y con el partido socialista de euskadi que eta nunca debió de existir mostramos nuestro compromiso

con las víctimas del terrorismo por lo tanto hemos firmado una transaccional que no es la que nosotros habríamos elaborado que no es lo suficientemente contundente pero que en esta ocasión

apoyada por todos los grupos democráticos de esta cámara

ya digo son los gobiernos quienes deben liderar la deslegitimación política ética y social del terrorismo y de sus ideas necesitamos gobiernos claros y contundentes señor lehendakari no un gobierno vasco

excarcelaciones masivas ni ante homenajes habidos en las últimas semanas a presos etarras excarcelados que es lo que ha hecho usted señor lehendakari y su gobierno yo hace quince días le preguntaba qué es lo que iba a hacer el gobierno para impedir homenajes a presos de eta

homenajes falso ya al menos se había producido un homenaje público

iba a impedir cualquier tipo de homenaje se me acusó de demagogia

de una gravedad mayúscula necesitamos un gobierno claro un gobierno contundente que diga que va

excarcelados se han lavado ustedes las manos durante estas semanas ya había habido un homenaje a un preso de eta excarcelado

ha habido más por lo tanto necesitamos gobiernos que cumplan y hagan cumplir la ley la ley de víctimas vasca la ley de víctimas nacional la constitución española y también la ley de partidos

gobiernos que cumplan y hagan cumplir la legalidad vigente incluida la ley de partidos que a día de hoy no se está cumpliendo por lo tanto el asunto es no tanto qué es lo que hacen los servicios auxiliares de eta

ese mundo que ha venido acompañando durante largos años las acciones criminales de eta en nuestra opinión lo importante es qué hacemos los demócratas para

la justicia y la verdad de lo que ha ocurrido este es el asunto no preocuparnos tanto de lo que hacen los que no son demócratas sino sobre todo ocuparnos

definitiva y evidentemente se trata de cumplir la ley y hacer cumplir la ley ni siquiera hemos sido capaces ya en euskadi en los últimos años

un día de la memoria para homenajear y recordar a las víctimas del terrorismo y esto es una cosa nuestra esto es una cuestión de los demócratas ni siquiera hemos podido hacer porque ha habido diferentes partidos políticos que han boicoteado por lo tanto es qué somos capaces de hacer nosotros evidentemente se puede elaborar

o se podría haber elaborado un plan de convivencia para deslegitimar el terrorismo de eta de manera contundente se puede elaborar un plan de convivencia para intentar buscar la equidistancia entre eta y el estado que es lo que ustedes han hecho o un plan de convivencia contundente y claro las instituciones democráticas evidentemente cuando se le encarga la elaboración de un plan de convivencia al señor jorge fernández lógicamente

de qué es lo que debe contener ese plan por lo tanto en nuestra opinión lo importante es qué hacemos los demócratas y qué hacemos o qué hacen nuestros gobiernos para deslegitimar el terrorismo de eta en nuestra opinión

los gobiernos no están haciendo todo lo que deberían no han hecho todo lo que deberían ni mucho menos para lograr esos objetivos por lo tanto

gustado que pudiera haber recogido esta transaccional en todo caso

recoge principios absolutamente fundamentales y por eso nosotros no hemos querido dejar de firmarla y de votarla

al partido nacionalista vasco al otro partido político democrático de que ya que no ha firmado esta transaccional al menos la vote finalmente parece ser que no va a ser así

entre los que defienden a eta y los que pretendemos deslegitimar de manera contundente a eta

aquí no valen abstenciones la posición del partido nacionalista vasco debería ser clara y concisa

gracias señora presidenta señorías egun on buenos días

los socialistas vascos no tenemos ningún inconveniente en entrar en el debate que ustedes nos proponen

pero nos permitirá que le recordemos que lo que usted nos propone ha sido debatido y votado en muchas ocasiones en este parlamento y en otras instituciones este debate

por los problemas y necesidades que tiene el pp que por la necesidad de reiterar esos acuerdos porque ustedes se han visto obligados

medios de comunicación o incluso algunos afiliados de su partido que se han enfadado mucho especialmente con ustedes

como consecuencia de la sentencia del tribunal de derechos humanos sobre la llamada doctrina parot y nosotros

incluso comprendemos el enfado y la posición que mantienen las víctimas del terrorismo y otras personas pero los partidos políticos

de hacer pedagogía democrática de explicar los límites de la ley

de justicia en una democracia pero dicho esto no tenemos ningún inconveniente

que hemos alcanzado una transacción con ustedes y con upyd para

reiterar la defensa de la democracia y el estado de derecho de los principios y valores en que se asienta la democracia y el estado de derecho entre ellos

el respeto al pluralismo político y social y los derechos de ciudadanía pero también en segundo lugar queremos

y por lo tanto la necesidad de aprovechar ese nuevo tiempo para avanzar y asentar la convivencia en tercer lugar queremos

desaparezca definitivamente y también dejar muy claro

trabajar por la convivencia con seguir pretendiendo

la violencia terrorista el futuro de la sociedad vasca desde nuestro punto de vista no se puede construir desde la amnesia el borrón o la cuenta nueva

recordando el daño causado el dolor y el sufrimiento que el terrorismo ha provocado en la sociedad vasca recordando a las víctimas y desarrollando una política de memoria verdad y justicia pero hemos conseguido que eta abandone todas las actividades terroristas y hemos conseguido

apoyo justificación y cobertura aunque sea por táctica apuesten por respetar la legalidad

y tenemos todos que reconocer que muchas cosas para bien han cambiado en euskadi

que ahora tenemos que consolidar porque antes eta asesinaba y ahora no antes los empresarios pagaban el llamado impuesto revolucionario y ahora no lo pagan antes muchos vascos y vascas

antes había espacios públicos de impunidad ocupados solo por los radicales

y ahora los hemos recuperado para el disfrute de todos antes había miedo

y ahora todos subrayo todos tenemos la oportunidad de defender abiertamente

antes el terrorismo era la principal preocupación de los vascos y ahora todas las encuestas de opinión han dejado de recoger que sea ni siquiera un problema

la acción de eta estaba en el centro mismo del debate político de este país y hoy afortunadamente por mucho que algunos se empeñen en el centro del debate político está

y aquello que realmente le preocupa de verdad a la ciudadanía antes había kale borroka violencia callejera sistemática planificada y organizada y hoy prácticamente esa kale borroka esa violencia callejera ha desaparecido es verdad

con todos los instrumentos que nos da el estado de derecho antes había una fuerza política que no estaba en este parlamento porque no aceptaba las reglas del juego del sistema democrático

insisto aunque sea por táctica aceptando todas las reglas de juego del sistema democrático

por eso tenemos que decir que estamos mejor que antes y lo digo porque estamos disfrutando de las libertades recuperadas

y transitando un camino de normalidad democrática y poniendo las bases para consolidar la convivencia

y hoy estamos mejor que ayer nosotros nos alegramos y todos deberíamos alegrarnos de ello y tenemos que recordarlo y lo hemos hecho los socialistas para no caer en el desánimo y en los discursos fatalistas que

y siembran alarmismos injustificados porque no deja de ser extraño que después de dos años sin terrorismo nos dediquemos a hablar de eta tanto como cuando eta mantenía todos sus actividades terroristas y asesinaba y por lo tanto

que es necesario combatir esos comportamientos fatalistas porque no es verdad como dicen algunas voces que eta

es radicalmente falso ha ganado el estado de derecho ha ganado la democracia ha ganado el conjunto de la ciudadanía vasca que venía peleando por conseguir

en euskadi eta es evidente

desaparezca sin ninguna contraprestación y que

reconozca los errores de su pasado sí y se incorpore plenamente al sistema democrático y asuma los valores del sistema democrático institucional y política con carácter permanente pero nosotros pensamos que estamos mucho mejor que antes y que hay que combatir insisto esas aptitudes fatalistas y señorías

basada como ya he dicho en la democracia el estado de derecho y en valores éticos y democráticos y en este objetivo este objetivo es absolutamente incompatible con que se pretende justificar por ejemplo el pasado negro y macabro

o de batasuna porque ese pasado hay que recordarlo era aquel en el que ellos gritaban eta matalos

ese pasado es el de la ponencia oldartzen la ponencia para socializar el sufrimiento que daba cobertura y justificación

eta ejecutaba ese pasado

y amenaza a concejales periodistas jueces o empresarios un pasado en el que solo no repudiaban y condenaban o rechazaban las acciones de eta sino que las justificaban

es el pasado que ustedes se han comprometido a superar en el acta fundacional de su partido por eso una vez más los socialistas reclamamos que sean coherentes

que hagan pedagogía democrática en su mundo que se pronuncien colaboren y eviten los rebrotes de kale borroka de violencia callejera que se han producido estos días en euskadi que eviten la agresión a sedes de partido políticos les emplazamos a que colaboren también y no apoyen

como se están produciendo en algunos casos porque por mucho que se quiera retorcer el lenguaje son homenajes cuando una persona sale de la cárcel

como ex terrorista de eta y es recibido en las calles con aplausos con vítores

y por eso además hay que dejar muy claro que lo que se está haciendo es mandar un mensaje de que lo que hizo estaba bien y esto tenemos que combatirlo tenemos que dejar claro que estuvo mal que nunca ha habido justificación ni antes ni ahora

se podrá decir lo que se quiera pero va claramente en contra de lo que dice la ley de reparación y reconocimiento de víctimas del terrorismo por eso es imprescindible que

acabo señora presidenta lo que hoy vamos a someter a votación lo hemos discutido y aprobado en muchas ocasiones en este parlamento por eso yo emplazo al partido nacionalista vasco y al lehendakari a que también hoy

porque aunque sea reiterar lo que hemos hecho es mejor que mostrar la división entre nosotros

a que sean coherentes en la defensa del estado democrático de los valores éticos y democráticos que hemos acordado

a que no se refugien en la defensa de los instrumentos y ante

y esa es la enmienda de totalidad que hemos presentado

la capacidad de iniciativa de todos los grupos parlamentarios lo décimos

todos los temas y las cuestiones que afecten a paz y convivencia porque así lo decidió este parlamento se traten en la ponencia que para eso se creó porque podemos concluir directamente sin entrar en los pormenores de las propuestas hechas de las manifestaciones vertidas

en este previo que no interesa tanto trabajar en la ponencia porque la ponencia exige pues evidentemente trabajar proponer

y hasta compartir claro no está expuesto en un escaparate público ese trabajo sin embargo la sesión plenaria sí

ruido y cuanto más mejor decibelios desafío escándalo pues

al menos no es la nuestra y queremos que lo sepan no es la vía

se ha dicho aquí que posicionamientos idénticos o similares se han producido en cantidad de ocasiones en sesiones plenarias pero ha llegado el momento de que también en un ejercicio de responsabilidad política

repito tal y como recoge la enmienda por eficacia abordemos todas estas cuestiones en los órganos que hemos definido y decidido a esos efectos es el caso de la ponencia de paz y convivencia esa es nuestra posición

que si se incorporan a la ponencia al día siguiente podemos tratar también estos temas que han sido tratados están deliberados y decididos

pero al parecer no interesa pues no cuenten con nosotros para ese viaje no es la vía vuelvan a la ponencia

los problemas que le crean ciertos sectores que tiene aún más a la derecha

este parlamento para ello nos parece que es una utilización errónea de un instrumento institucional el mundo maría san gil

y toda la extrema derecha le están presionando

sean capaces de adquirir posición política propia con respecto a lo que está pidiendo la sociedad vasca en este momento y den pasos adelante para ello tienen instrumentos psek

que no sabe dónde tiene la izquierda y la derecha no entendemos el mensaje que hace y no entendemos que aunque diga que estamos en una fase política nueva sus hechos demuestren todo lo contrario el señor ares nos anunciaba hace poco que está de retirada

y de construcción de la convivencia democrática está dos pasos más atrás

ya ni le vemos y un consejo para el partido socialista

se mueve cuando la presionan le aconsejo que pruebe a hablar con ellos y con ellas

y que cuando se habla es más fácil que todos nos podamos mover horretarako mugitu ahal izateko guztiok

presidenta si el problema de la moción de hoy es qué grupo la ha presentado

se la regalo la presenta ustedes la presenta el grupo socialista

se la regalo yo no vengo aquí a competir en nada yo vengo aquí a traer la realidad de la sociedad vasca

y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo en que la sociedad vasca está mirando al futuro a un futuro democrático

por fin puede mirar al futuro a un futuro

y qué es lo que me han dicho silencio aquí tiene que haber silencio es fundamental

y yo me pregunto por qué por qué porque su argumento

se le puede dar la vuelta cuál es el problema para que hoy aquí

a la situación real que está viviendo euskadi este parlamento no se pueda pronunciar en algo tan sencillo

cuál es el problema no nos engañe si ustedes saben que esa ponencia significa el desencuentro significa el desacuerdo y lo saben aquí en este momento es donde podemos llegar a un acuerdo pero han ido a lo fácil al recurso fácil ustedes tienen problemas

ustedes tienen problemas porque ha querido aquí quedarse con la forma la forma es que

todo en la coctelera de la ponencia arregladito arregladito para qué

y usted lo sabe lo sabe perfectamente pero es que también ha deslizado que tiene problemas con el fondo y eso es lo que a mí me preocupa porque hace poco aquí el lehendakari dijo que no tenía ningún problema con decir que eta nunca debió

o sí tiene problemas lehendakari porque ahora sí tienen problemas ustedes con aprobar esto aquí

sí y nos piden silencio silencio eso es lo que están pidiendo

y no hacer la revisión que usted sabe que es necesaria que se haga en esta sociedad y que haya un reconocimiento y que desde las instituciones se diga

claramente que esta sociedad deslegitima el terrorismo y cualquier

una situación parecida ese es el problema y vienen aquí a decirnos que nosotros tenemos un problema

eso es y que usted debería liderarlo lehendakari y le estamos diciendo que usted tiene hoy el mandato democrático de liderarlo

tiene ese mandato para liderarlo y parece que lo único que quiere liderar es que esto se mantenga es que todo esto se mantenga en el tiempo en que no avancemos

lehendakari y se lo digo hoy ustedes se están convirtiendo en los que entorpecen poder avanzar realmente en una sociedad democrática plena que deje atrás el pasado del terrorismo y puede ocurrir lehendakari que ustedes pierdan esta oportunidad

sí gracias presidenta creo que ha habido algún portavoz que ha dicho que vivimos en un momento crucial de nuestra historia

defender la libertad de defender la democracia

se trata de defender todo esto y hacerlo tantas veces como sea necesario no hay ningún problema en que este parlamento se posicione a favor de estos principios democráticos no debería haber ningún tipo de problema en este caso ha sido el grupo popular quien presentó la interpelación y la correspondiente moción nosotros no tenemos ningún problema en ello hablamos de cualquier tipo de asunto

vivimos un momento crucial se trata de defender la justicia y de evitar e impedir cualquier tipo de impunidad

fundamental y el partido nacionalista vasco no debería ponerse otra vez de perfil

señor ares señores parlamentarios sigue habiendo ciudadanos escoltados sigue habiendo para la impunidad a pesar de que aquí se ha dicho básicamente lo contrario sigue habiendo miedo en parte de la sociedad vasca sigue habiendo o ha habido en las últimas semanas episodios de kale borroka y sigue

y no solo eso sino que las víctimas del terrorismo están extraordinariamente preocupadas muchas víctimas del terrorismo y buena parte de la sociedad vasca y española está inmensamente preocupada por lo que estaba ocurriendo en los últimos meses muchas de ellas se sienten traicionadas y abandonadas por los diferentes gobiernos y por esto debe hablarse de todo esto también aquí en sede parlamentaria en abierto

para que los ciudadanos sepan perfectamente qué es lo que defendemos

ningún problema en posicionarnos sobre este tipo de cuestiones tantas veces como sea necesario y defender las mismas cosas que hemos venido defendiendo durante los últimos cinco años

de las cosas que han venido ocurriendo en los últimos tiempos ha habido presos de eta excarcelados pero ha habido presos de eta excarcelados apresuradamente de manera innecesaria apresuradamente y ahí hay también responsables ha habido presos de eta excarcelados injustamente

no hicieron todo lo que estaba en su mano para impedirlo a través de las modificaciones legales correspondientes

hay presos de eta no arrepentidos que se han beneficiado en nuestra opinión de manera sorprendente de beneficios penitenciarios presos de eta no arrepentidos que se han beneficiado de manera

de beneficios penitenciarios y de esto también hay responsables ha habido señor lehendakari homenajes públicos a presos de eta excarcelados aunque usted lo niegue los ha habido y por lo tanto hay también responsables políticos

estos homenajes no solamente por no haber impedido estos homenajes sino por haber dicho en sede parlamentaria que no había habido homenajes por atacar a un grupo político minoritario que llamó la atención sobre este hecho

no solamente que ya se había producido un homenaje sino que se iban a producir más y hay responsables políticos y ese responsable político señor lehendakari es usted por no haber impedido esos homenajes y hay evidentemente

que ha día de hoy incumplen claramente la ley de partidos y están legalizadas e incluso tienen presencia en esta cámara y también de esto hay responsables políticos hay responsables por lo tanto a nosotros nos parece perfectamente razonable que de esto también se siga hablando con luz y taquígrafos en abierto para que los ciudadanos sepan qué es lo que pensamos y qué es

políticas nosotros vamos a seguir denunciándolo políticamente y jurídicamente hemos denunciado ante la audiencia nacional que ha habido seis homenajes públicos a presos de eta excarcelados nosotros no vamos a callarnos nosotros no vamos a mirar para otro lado hemos ido a la audiencia nacional

a decir que ha habido homenajes y nuestra obligación es seguir denunciando políticamente también en este parlamento

y que no van en la línea de deslegitimar el terrorismo de eta sino más bien todo lo contrario ya digo no vamos a callarnos no vamos a callarnos y en todo caso este parlamento señora quiroga hoy se va

cada grupo político se va a posicionar nosotros nos vamos a posicionar a favor de la derrota de eta en contra de cualquier tipo de impunidad vamos a posicionarnos claramente a favor de la derrota de eta algunos parlamentarios de esta cámara y lo cierto es que el partido nacionalista vasco como siempre

gracias señora presidenta señor egibar la ponencia de paz y convivencia

la impulsamos los socialistas y dio buenos frutos fuimos capaces de acordar y dejar preparado para esta el denominado suelo ético y democrático que después ratificamos en este parlamento

con la voluntad de seguir avanzando y seguir llegando a acuerdos pero la realidad es muy tozuda y se puso claramente de manifiesto como luego diré que no había condiciones objetivas para que fuera útil

por eso lamento profundamente que hoy su partido

como ya he dicho los acuerdos que hemos alcanzado en otras ocasiones que una vez más le facilite el escapismo al mundo de

que no entiendan que es necesario sí mantener la exigencia hacía ese mundo lamento que se refugie en la defensa del instrumento que esto es lo que es

y convivencia que ya se ha demostrado que no era útil ni viable a defender los principios los principios que durante mucho tiempo todos hemos compartido y espero que sigamos compartiendo mire si no había condiciones en septiembre como le dijimos en muchas ocasiones

mucho menos los hay ahora especialmente después de oír como destacados dirigentes de sortu defienden con orgullo sí con orgullo

ese pasado donde se gritaba eta matalos y eta mataba ese pasado de la ponencia de la socialización del sufrimiento que daba cobertura a las acciones de eta ese pasado que ustedes señorías de eh bildu tienen que

y ser capaces de superarlo reconociendo el daño y el dolor el sufrimiento que han causado en la sociedad

no lo son por mucho que se empeñe señoría ponga todo el esfuerzo en defender los principios y los valores que compartimos

nosotros vamos a seguir siendo exigentes con ustedes es que la costumbre del debate con el señor arzuaga siempre

vamos a valorar positivamente como lo hemos hecho los avances que ustedes vayan dando las decisiones que adopten para recorrer el camino que a nuestro juicio tienen que recorrer

quieren tomar decisiones para avanzar para de verdad poder trabajar para consolidar

pero es radicalmente incompatible querer trabajar para asentar la convivencia y las libertades con algunos comportamientos

que ustedes mantienen en su práctica institucional y diaria y simplemente tendrían que hacer algo que nosotros le reclamamos permanentemente es ser coherentes con lo que se han comprometido en el acta fundacional de su partido señor arraiz

con lo que se han comprometido en la práctica diaria

y si lo hacen seguramente habrá condiciones para que puedan hacer una revisión autocrítica de su pasado podamos de verdad poner las bases para trabajar juntos para construir el futuro y asentar la convivencia mientras sigan queriendo

mientras no asuman que es imprescindible también para asentar la convivencia reclamar a eta que tiene que disolverse

mientras no entiendan que es necesario hacer política de memoria verdad y justicia para todas las víctimas también y especialmente para las víctimas de eta

para poder entendernos mire yo le emplazo

y a que salga de las justificaciones que en muchas ocasiones ustedes tienen para no comprometerse

de acordar una declaración muy sencilla en este parlamento una declaración donde se recoja claramente se lo digo en primer lugar para su satisfacción

el rechazo y la condena a todas las actividades terroristas si quiere en su denominación el terrorismo de estado gal

y sí también el rechazo repudiar condenar

podrían suscribir este acuerdo el problema es usted puede hacerlo si puede hacerlo es cuando de verdad estaremos dando pasos importantes

señores en lo que se refiere a la ponencia no lo he dicho yo

idiomas oficiales en euskera ha dicho que

que la ponencia desarrolle sus trabajos sobre el suelo ético aprobado en la legislatura pasada y ratificado en este pleno el mes de marzo lo han dicho ellos no les dejamos modificar ni una coma

y usted se empeñó en votarlo y lo votamos y sabe usted dónde estaba la famosa diferencia la memoria como instrumento deslegitimador del terrorismo y dijeron bien

y pongan y de todas las violencias y les dijimos efectivamente eso está incluido

ya veremos en el desarrollo de los trabajos si somos coherentes o no con esos principios ese era el marco de juego después ustedes no sé qué reflexiones han hecho y a qué conclusiones estratégicas han llegado el pasado verano o el postverano ese mes de septiembre del que tanto habla alguna decisión estratégica han adoptado con respecto a la izquierda abertzale pero ese era el trabajo desarrollado hasta entonces es así

ha fijado la mirada en el pnv yo no he hablado que usted tenga problemas

yo le he dicho a usted la comodidad o incomodidad que al parecer tienen

en ponencia donde se compromete el esfuerzo y el trabajo la comprensión incluso poder compartir o participar con otras formaciones políticas ustedes saben que tenemos un suelo sólido

porque prefieren la exhibición la actuación y sobreactuación en muchas ocasiones

con un enunciado que desde luego está en el adn de nuestro partido por un lado politikan aritzeko herrigintzan aritzeko

principios claros metas fijadas y evidentemente

es lo que está aplicando es en lo que está invirtiendo el partido nacionalista vasco ustedes saben cuál es nuestra posición con respecto a todos y cada uno de los puntos

en la ponencia y en otros ámbitos también saben saben de nuestra vocación de este gobierno del lehendakari lo saben

en negar esa realidad hori da gure benetako bokazioa claro nosotros venimos hacer un chequeo un chequeo democrático a esta cámara hemos presentado una enmienda

sí sí parlamentarios este es un chequeo

no representamos aquí el voto popular cada uno en su proporción evidentemente que sí y nosotros tenemos nuestros veintisiete y hoy preguntamos a la cámara si la ponencia sirve o no sirve sirve o no sirve

ustedes verán exactamente por qué se van a posicionar en contra de eso porque al día siguiente pueden meter la moción esta

por qué no lo hacen por qué no lo hacen no les interesa tanto el compromiso que derivaría

y prefieren la exposición pública el desafío permanente a poder ser con escándalo repito no es la vía al menos no es la nuestra

irakurtzen behintzat ikasten duen un poco de lectura comprensiva por un lado

a ver si distingue entre lo que pone y lo que usted se imagina eso por un lado por otro lado algún día si tengo la oportunidad le traeré la ponencia oldartzen y comprobará

no aparece en toda la ponencia a ver si dejamos de hablar de oídas

en base a lo que leemos realmente eta bestela zuei ere

muchas gracias señora presidenta buenos días señorías lehendakari miembros del gobierno egun on

que mi iniciativa aquella y esta eran eminentemente constructivas

seguramente no intencionado por el que el concepto y por ende el alcance

ese acuerdo tenía el propósito anunciado de la reactivación económica y del empleo y su fin en líneas generales su declaración de intenciones era que el acuerdo

sostenible y competitiva eso ponía pero la economía social y solidaria no aparecía como especificación y como propuesta de actuación y desarrollo concreta solo una simple mención a las cooperativas en la parte fiscal además hace que ese

insuficiente como un pequeño desequilibrio con una ausencia conceptual importante desde nuestro punto de vista

las concreciones son importantes porque demuestran compromisos demuestran voluntades y quien redactó el acuerdo

no se percató de un olvido a la hora de tratar de ser integrales en el abordaje de las necesidades para esa aludida reactivación económica y del empleo la economía social estaba ausente

yo no voy a reproducir todo lo debatido en la interpelación hace un par de semanas entre el consejero y este parlamentario el nivel de sintonía es grande en esta y yo le dije vuelvo a repetir que yo quería ayudar al gobierno el ejecutivo tiene que desarrollar el acuerdo suscrito el dieciséis de septiembre todo indica que ese documento es una hoja de ruta para

y por eso en ese espíritu de ser constructivos mi grupo una vez más detectado el error quiere que no pase desapercibido está claro que no lo hará

la acción de oposición de mi grupo que velará porque eso no ocurra porque la economía social esté

como recordaba el otro día tenemos pendientes algunas cuestiones un próximo debate de la comunicación encargada al gobierno sobre economía social

desde luego un debate importante legislativo en lo que será la reforma de la ley de cooperativas o la ley que venga de economía social a este parlamento

importante en nuestras enmiendas al presupuesto donde mi grupo también incide en fortalecer algunas partidas contempladas en la dirección de economía social

en el congreso de los diputados en dos mil once y aún pendiente de desarrollo efectivo y otras cuestiones importantes como es ir dando pasos en los acuerdos y convenios

con el consejo superior de cooperativas también con el resto de empresas de economía social y colectivos que los representan vuelvo a decir la interpelación y la moción

y constructivo de la acción parlamentaria queremos criticar el olvido pero sobre todo llamar la atención sobre el mismo para que ese error

son muchas cooperativas sociedades laborales

centros especiales de empleo mutuas epsvs sociedades cooperativas pequeñas sociedades agrarias de transformación cofradías de pescadores la irrupción del concepto empresa pft participada financieramente por los trabajadores

como relevante el papel que muchas fundaciones o asociaciones de utilidad pública tienen en el ámbito económico pues ellas todas ellas todas estas son relevantes son imprescindibles para el futuro económico y social ese futuro económico y social potente y desde luego identificadas como factor propio de interés específico y declarado en el documento al que yo me hacía referencia antes y que comentamos y lo tratamos en la interpelación tenemos que recordar que dos mil doce fue el año mundial de las cooperativas y lejos de que el protagonismo de la economía social se redujese a esa fecha se redujese a dos mil doce como año internacional como declaración de intenciones

rico en pronunciamientos internacionales y en planes de trabajo y actuación de cara al futuro en relación con esta fórmula económica con la economía social naciones unidas ha constituido un grupo de trabajo sobre economía social y solidaria es decir este grupo interinstitucional se creó el pasado treinta de septiembre

y que tiene como objeto ese grupo interinstitucional tiene como objetivo entre otros muchos mejorar

y organizaciones de la economía social y solidaria entre otras bueno eso conecta con lo que nosotros pedimos aquí ese esfuerzo de las naciones unidas otro esfuerzo importante la comisión europea

con los países euro mediterráneos anuncia recientemente medidas para favorecer la economía social recogiendo las propuestas que presentó la red euro mediterránea de economía social es decir ahí el papel es reforzar la economía social

en las que nosotros nos tenemos que mover nos queremos mover y otra una tercera pata de esas resoluciones importantes

pasado del parlamento europeo sobre la contribución de las cooperativas y de otras empresas de economía social con una serie de reconocimientos en esa resolución inequívocos y del papel de esta modalidad económica como favorecedora del emprendimiento y la reactivación

con lo que nosotros estamos manifestando y estamos defendiendo y con lo que es ese olvido referencial o conceptual del que yo me hablaba y que desde luego queremos subsanar en la práctica parlamentaria y esperemos que en la práctica de gobierno bien a todo ello nos referimos en nuestra moción el primer punto

vuelvo a decir es constructivo demuestra que es necesario que se constate un pronunciamiento que el texto del acuerdo no tiene y eso que sea asumido por el gobierno

insta al gobierno vasco a que tenga al conjunto de la economía social como una de las principales referencias a la hora de desarrollar el acuerdo para conseguir una euskadi más moderna solidaria

contemplará el fomento y difusión de la economía social y desarrollará programas y actuaciones encaminadas a su consolidación y avance nosotros aquí no hablamos de olvidos aquí hablamos de avances hablamos de impulsos y que hacemos esa referencia efectivamente nombramos al acuerdo porque va a ser un instrumento de referencia

de avance y de consolidación de la economía social

punto porque en él décimos que el parlamento vasco se suma

el papel de la economía social en ese sentido considera relevantes entre otras la resolución del parlamento europeo la de dos de julio de dos mil trece

así como la constitución del grupo de trabajo interinstitucional de las naciones unidas sobre economía social constituido el treinta de septiembre de dos mil trece en ginebra seguramente que hay más de hecho en relación con organizaciones con ámbitos defensores de la economía social y que tienen incidencia y que tienen un papel de referencia en

eran de referencias actuaciones importantes son actuaciones de referencia en los ámbitos

se puede influir como es el nuestro el de nuestra actividad institucional política económica y social

sumar a los mismos y le hemos puesto ahí y en tercer lugar

los pronunciamientos que a través de las proposiciones no de ley y de las resoluciones de los debates sobre comunicaciones de gobierno

difusión de la economía social y solidaria y se insta al gobierno a que junto con los representantes del sector establezca los acuerdos y convenios necesarios para fortalecer y desarrollar programas de actuación y apoyo hacia esa expresión esencial de la economía europea lógicamente en consonancia

parece que efectivamente la mayoría parlamentaria ha decidido hacer una enmienda de totalidad

lo planteado de alguna manera o el punto del asunto que nosotros planteábamos

con la moción en consecuencia de interpelación pero bueno es lógicamente asumible vamos

hecho el esfuerzo de hacer una enmienda de transacción será aprobada la enmienda de totalidad ya que parece ser que

nuestra moción pero en cualquier caso los tres puntos son lógicos y seguir impulsando la economía social como sector prioritario eso ya lo decía yo a gestionar con celeridad el cumplimiento de las resoluciones

lo que tenemos que hacer ya establecer con los representantes de las diferentes formas empresariales acuerdos y convenios pues también lo decía yo efectivamente

decía más cosas y creo que acertábamos

en cualquier caso el pronunciamiento del parlamento seguirá siendo de avanzar en relación con la economía social

para finalizar seguir recordando mi grupo ha detectado ese error

firmado por el partido nacionalista vasco y el partido socialista ha detectado el olvido y lo ha querido

a través de la interpelación a través de las iniciativas parlamentarias a través de la moción también hemos presentado enmiendas constructivas al presupuesto en relación

de fortalecimiento del emprendizaje en economía social y de las acciones institucionales de estudio de análisis de fomento de la economía social

lo veremos en el debate pero también hemos querido poner de manifiesto la importancia del sector también lo hemos querido hacer

y por ello en el acuerdo firmado entre el gobierno vasco y el grupo parlamentario popular vasco para los presupuestos generales de dos mil catorce nosotros hemos querido ser claros nosotros

acertadamente y el gobierno también ha incluido en el capítulo de compromisos

es el que falta o una de las expresiones que falta en el acuerdo del dieciséis de septiembre del partido nacionalista vasco y el partido socialista

con el gobierno vasco se dice lo siguiente los suscribientes también reconocen la relevancia del movimiento cooperativista y la economía social en general tiene en la comunidad autónoma vasca

solidaridad crear puestos de trabajo de calidad reforzar la cohesión económica y regional y captar capital social a cuyos efectos se comprometen a adoptar las medidas de fomento impulso y difusión oportunas

es un párrafo pero es un compromiso y es una declaración de intenciones

subsana un olvido clamoroso muchas gracias señora presidenta

gracias presidenta lehendakari jauna consejeros señorías buenos días

bien comenzando por el principio yo le niego la mayor señor barrio en el acuerdo que firmó el partido socialista de euskadi el pasado dieciséis de septiembre para conseguir esa euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva

la economía social en el mismo sino que está referenciada en el anexo para la reactivación económica y el empleo y también en el segundo anexo sobre reforma tributaria fiscalidad y lucha contra el fraude lleva tiempo el partido popular intentando el acuerdo firmado entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco

si es para dar más importancia a sus propios pactos presupuestarios o es un intento un tanto desesperado del propio partido popular por hacerse notar al llegar a los pactos entre partidos

de forma parcial y renqueante y lamento que el partido popular no haya entendido ni el por qué ni el alcance del acuerdo que firmó el partido socialista en septiembre y voy a intentar ya que su iniciativa me insita a ello a ponerle al tanto del mismo

cuando el partido socialista de euskadi propone al partido nacionalista vasco negociar

ante la constatación del fracaso de gobierno del lehendakari urkullu que estando en minoría fue incapaz de buscar acuerdos con nadie

y es a partir de ese momento cuando los socialistas proponemos negociar acuerdos más allá de los presupuestos negociación que culmina ese dieciséis de septiembre con la firma del acuerdo para conseguir una euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva con el partido nacionalista vasco y que el lehendakari urkullu ratifica con su compromiso de llevarlo a la práctica

que hay momentos en la política que si se ejerce con responsabilidad tiene que dejar a un lado los agravios

en beneficio de la sociedad a la que se quiere representar y eso es este acuerdo señor barrio un acuerdo político en beneficio de la sociedad vasca que busca dar respuesta a los problemas reales que tiene la ciudadanía y por eso es un acuerdo tan importante como necesario porque sirve a los trabajadores y a los empresarios

porque sirve a los desempleados y a los emprendedores porque garantiza el sostenimiento de los servicios públicos y de las políticas sociales en euskadi políticas por otra parte

el partido popular está intentando desmantelar allí donde gobierna y por eso

con esta y otras iniciativas anteriores de pasadas semanas

político y social enorme porque con él somos capaces de dar utilidad a la política

que es lo que siempre debiera ser y este acuerdo es importante y fundamental para la sociedad vasca porque es un acuerdo que sirve para reactivar para incentivar la economía para generar empleo con planes y propuestas específicas para ello

sin ningún tipo de merma ni de recorte este señor barrio es un acuerdo para definir un país y una administración más moderna y razonable sin duplicidades y un país con una fiscalidad que dé soporte a todo esto desde los parámetros de justicia

y progresividad y este acuerdo firmado por los socialistas vascos solo olvida y de forma consciente la resignación ante la crisis y ante los recortes del estado del bienestar y por eso no admitimos lo socialistas vascos

acusar de olvidar o excluir de este acuerdo a la economía social primero porque no es cierto y en segundo lugar porque hemos sido los socialistas

al que consideramos un contrato ciudadano como en los plenos monográficos de fiscalidad

que se celebraron en los meses de febrero y marzo de este mismo año digo plenos monográficos en esos plenos quienes propusieron resoluciones específicas con nombre y terminología específica de economía social fuimos los socialistas y el partido popular no presentó ninguna referencia ninguna en ninguno de los dos plenos por lo tanto qué paso señor barrio qué le pasó al partido popular en el mes de febrero y de marzo cuando se tratan en plenos monográficos de calado

y sobre el tema del incentivo de la economía y el empleo qué le pasó al partido popular para que no se le ocurriera el famoso tema de incluir el concepto de economía social

alguien les ha pedido explicaciones de por qué semejante olvido bueno pues seamos serios primero porque quienes forman parte de la economía social las cooperativas las mutualidades las fundaciones las asociaciones que llevan a cabo actividad económica las sociedades laborales las empresas de inserción

etcétera no se excluyen del concepto de economía que hay en ese acuerdo y cuando se trata en el mismo del impulso de la economía productiva

que ambas partes compartimos que la prioridad hoy en euskadi es incentivar la economía facilitar crédito y ayudar a las empresas a crear empleo y para ello se impulsará un plan para la reactivación económica y el empleo dotado con cinco mil setecientos cuarenta millónes de euros

y un programa de estímulo empresarial para asegurar financiación a través de avales a las empresas con proyectos solventes que creen y generen empleo en euskadi

por qué considera usted que está excluida y por qué considera que la medida de establecer un fondo en euskadi para dotar de capital a nuevas iniciativas empresariales

no está pensada también para la economía social por que la economía social está excluida del anexo primero sobre activación económica y empleo cuando prácticamente

forman parte de los principios de la economía social y cuando las medidas a favor de la inversión y de la innovación tecnológica y no tecnológica se dirigen al fomento de las iniciativas empresariales y ya el colmo de los colmos es cuando usted pasa de dar la más mínima importancia

la falta de referencia específica a la economía social

sobre reforma tributaria se establece específicamente la deducción por participación de los trabajadores en la empresa en el impuesto de renta de las personas físicas o cuando en el impuesto de sociedades se hacen alusiones específicas a las cooperativas en lo que se llama tributación mínima y en la desgravación fiscal

y al hecho de que ustedes pactaron la cuestión fiscal e implantaron su firma también en ese acuerdo de forma parcial en ese ámbito exclusivamente de la fiscalidad yo me pregunto señor barrio cómo es posible que no hicieran la del partido popular

en economía social en ese pacto se le olvidó

porque en el acuerdo en su totalidad recoge ampara y referencia

también la economía social no se excluye señor barrio ninguna formulación u organización jurídica de empresa el partido socialista de euskadi ha reconocido y reconoce el valor presente y futuro de la economía social en euskadi y por eso tanto en

autonómicos los socialistas hemos hecho alusión a la economía social y es más

en los presupuestos del país vasco del año dos mil diez al dos mil once usted lo sabe consta que la economía social se gastaba y tenía a su disposición

euros exclusivamente para el programa de economía social

un avance y el fomento de la economía social porque de verdad creemos en la economía social señor barrio aunque a usted parece que a veces esto le pese porque valoramos y reconocemos el papel de las diferentes formas empresariales de la economía social vasca

para generar riqueza y bienestar en el país vasco y por eso ni entendemos ni compartimos la iniciativa del partido popular en el día de hoy

porque nadie además señor barrio perteneciente al sector de la economía social de la economía solidaria nos ha reprochado al partido socialista ningún representante nos ha reprochado ningún o falta de referencia a su sector a ese sector de la economía social al que pertenece el tema del acuerdo por una euskadi más moderna solidaria

la economía si no es social no es economia afirmazio edo baiezko batekin erantzutea

un olvido clamoroso hacia la economía social lo debemos de identificar como un error una laguna o una irresponsabilidad a la vista de la lamentable situación

eta errepikatuko dut zuk aurretik esandakoa como entiendo que la economía

no tengan ninguna duda sobre el impulso de este gobierno con la economía social comparto el hecho de que las personas aparezcan en la economía social como el principal valor a preservar frente al valor del capital

gracias señora presidenta efectivamente la importancia de los acuerdos vuelvo a decir en el acuerdo firmado

ayer un acuerdo entre el gobierno vasco y el grupo parlamentario popular sobre la aprobación de los presupuestos generales de euskadi para dos mil catorce

de economía social cuestión de la que no se habla en otros documentos o en otros acuerdos vuelvo a decir

ya es fundamentalmente constructivo lo que hemos tratado de hacer nosotros en la firma del acuerdo

deberes al gobierno pone deberes a los firmantes

de sostenibilidad efectivamente y de referencia económica el que se ha firmado y donde la economía social tiene

a desarrollar por el gobierno y eso es lo que pretendíamos señora corcuera si básicamente podemos estar de acuerdo no está claro que el tema como se dice vulgarmente les ha hecho pupa

hecho desde un ámbito constructivo no les ha gustado o yo entiendo que

a la vista de un acuerdo que se ha firmado y que tenía

subsanamos el error el olvido vuelvo a decir seguramente no malintencionado pero bueno lo tratan de englobar ahora en las explicaciones del conjunto de la economía como valor general y efectivamente

a los valores sociales es normal el emprendizaje sí pero miren

que hay que decir las cosas que si no se mencionan si no se conceptualizan se pierden se diluyen los compromisos se diluyen las voluntades

desde el ámbito más constructivo posible desde la mejor de las voluntades para que eso sea así usted habla del sector pues pregunte usted al sector si se ha decepcionada con esta ausencia es verdad lo que pasa el sector que engloba al mundo cooperativo al mundo de las sociedades labores el sector que engloba la economía social no mete ruido es prudente hace las reflexiones

pide a los demás que hagamos los esfuerzos y a algunos se les olvida o no lo recogen pero todo eso se puede arreglar es decir no es un sector que va a hacer denuncias públicas no

que quieren mejorar que hacen aportaciones que seguramente harán las aportaciones cuando nosotros debatamos en este parlamento la comunicación del gobierno o cuando debatamos los presupuestos o cuando debatamos el proyecto de ley de reforma de la ley de cooperativas o el proyecto de ley de economía social

señora corcuera en relación con esta cuestión y diga

con este olvido pero bueno vuelvo a decir yo no he

para ser constructivo para poner de manifiesto esa cuestión he querido poner de manifiesto ese tema esa incomodidad que ha surgido desde luego yo lo he constatado porque al fin y al cabo ha habido un reconocimiento de que eso no se menciona y eso ya es algo es un avance

este mismo debate independientemente de que podamos hacer

ya constante en la actividad parlamentaria de esta cámara acusar al partido popular de todos los males de nuestra economía y de la sociedad a mí lo que me ha servido este debate es para elevar el tono sobre esta cuestión elevar el tono conceptual no el tono político sino para entender que ese error ha estado ahí la economía social

de septiembre pero que en cualquier caso la posición del gobierno la aptitud del gobierno

como una prioridad y como una referencia bueno finalmente

los modelos económicos una especie de tótum revolútum en relación con la cuestión desde luego no ha entrado en la cuestión de fondo

decepcionante una vez más lo que es decepcionante es cuando habla la señora mintegi de sarcasmos la señora mintegi habla de sarcasmos sarcasmo señora mintegi es el apoyo

y social de tierra quemada que es la que obliga a que empresas como tubacex se marchen del país vasco por culpa de actitudes como la que usted representa muchas gracias

gracias presidenta señor barrio yo decepcionada no usted que no le va a salir la moción yo no

a plantear las propuestas y la posición del grupo socialista y mire señor barrio a mí me parece impropio y se lo digo de corazón me parece impropio que el partido popular

y además me parece impropio porque busca una excusa bastante inaudita la falta de referencia a la economía social que además señor barrio es que es falsa lo mire por donde lo mire es falsa se ponga usted como se ponga y se empecine y se ponga terco pues es que es falsa y se lo hemos demostrado

yo creo señor barrio que flaco favor se hace al impulso al fomento o a la visibilidad positiva de la economía social

acuerdo de país firmado por el partido socialista para una euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva un acuerdo que tiene además un valor

porque con él vamos a ser capaces de dar utilidad a la política y ser capaces además de ponerla al servicio de la sociedad en un momento especialmente duro complejo y difícil para toda la ciudadanía vasca ante la crisis política social y económica que estamos sufriendo la economía social se ve estoy convencida de ello perfectamente referenciada en ese acuerdo de país

las cooperativas las mutualidades las fundaciones las asociaciones que llevan a cabo actividad económica las sociedades laborales las empresas de inserción los centros especiales de empleo las cofradías de pescadores las sociedades agrarias de transformación etcétera no sé han dirigido

ni siquiera en privado ningún representante al partido socialista de euskadi para hacerle llegar la queja o el reproche que usted ha escenificado hoy aquí ni en público ni en privado señor barrio y los socialistas hemos apoyado en esta cámara y en comisión cuantas iniciativas a favor del fomento apoyo

se han tratado porque ese es nuestro compromiso con la sociedad a través de nuestro programa electoral porque fue un compromiso de gobierno en la anterior legislatura con más de quince millónes trescientos mil euros puestos a disposición de la economía social por el gobierno del lehendakari

y porque en nuestro trabajo parlamentario en los dos plenos monográficos que aquí tratamos

las propuestas que se hicieron y que además resultaron aprobadas

en esas resoluciones tanto en fiscalidad como en empleo eran resoluciones sobre economía social que los socialistas propusimos no el partido popular señor barrio pero este apoyo no significa que vamos a decir amén

o del todo vale con tal de que se hable de mi libro ahí no nos van a encontrar los miembros del partido popular hoy no buscaba usted

ningún acuerdo en esta cámara para favorecer el impulso de la economía social ninguno y usted lo sabe los socialistas lo que hemos buscado

en la acción política y estamos convencidos de que el acuerdo de país por esa euskadi para lograr esa euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva el dieciséis de septiembre es el instrumento más útil que hemos puesto a disposición de la sociedad vasca y por tanto también de quienes forman parte de la economía social para generar entre todos riqueza impulsar la economía y generar empleo en esa difícil coyuntura de crisis le pese a quien le pese

hubiesemos querido que se sumaran al mismo no ha podido ser gracias eskerrik asko corcuera andrea

esateko al señor carmelo barrio que me alegro que comparta el tema de los valores a los que hacía referencia y únicamente que a través de ese discurso lo que pretendía era

que el concepto de economía social que usted trataba de traer hasta aquí pues se ha desvirtuado y se haya llevado a debates interesados de otros aspectos

con lo que usted pretendía por eso hablaba antes de que

es cierto señor barrio la importancia del acuerdo no tengo ninguna duda acuerdo para qué

este es un acuerdo que han hecho dos partidos para dos partidos y se están empezando a ver los frutos se está empezando a ver el resultado

un acuerdo que permite por ejemplo que en aquel lugar donde los partidos políticos veían necesidad de hacer una enmienda a la totalidad

gobierno admite que el presupuestoque presentó para el dos mil trece es prácticamente igual que ha presentado para el dos mil catorce

de un acuerdo efectivamente entre partidos al cual se suman más personas otro un tercer partido

vemos que por virtud de un acuerdo se hacen enmiendas parciales conjuntas vemos que por virtud de un acuerdo en aquel lugar donde algunos decían que había que hacer marcha atrás

de los trabajadores públicos se firma lo contrario en ese acuerdo vemos que un partido que había pedido una comisión de investigación

con su voto permite que no tenga que interpelarse al lehendakari para que responda sobre esos temas es decir exactamente la importancia del acuerdo un acuerdo que lo que hace es empezar a pagar la cuota por pertenecer a un club a un club

un club donde se ponen una serie de prioridades y una serie de condiciones que van absolutamente en contra de esta economía social que estaban planteando

hablando de la economía social cuando luego se toman medidas concretas

y realmente me resulta difícil de entender cómo se hace una cosa y se dice otra me resulta difícil entender esa falta de coherencia ese discurso vacuo vacío que parece que hace función de placebo que viene solo a contentar pero que no da las soluciones evidentemente estamos en dos modelos políticos clarísimamente diferenciados dos modelos que

vemos aquí la plasmación de cómo entendemos esta sociedad

hay un modelo que entiende esta sociedad que hay que hacer continuismo de lo que se ha hecho hasta ahora y sabemos a dónde nos ha traído esta crisis no ha crecido de la nada

pretende poder responder a la señora que ayer me paró para decirme cómo nos vais a ayudar
y yo aquí no veo respuestas para responder a la señora isiltasuna mesedez para decirle cómo le vamos a ayudar
el acuerdo que como ustedes dicen es tan importante que firmaron antes de ayer

ni a todas las señoras y señores que están en esa situación porque están ustedes

a unos poderes políticos que son ávidos que son voraces y que en ningún momento tienen en la mente una política económica y social esa política económica que ustedes ya aquí están defendiendo de palabra